muchas gracias señora presidenta simplemente para agradecer al resto de grupos

de las suyas y no se pierden las viejas costumbres de los que evidentemente llevan toda su vida

que es en aras de la mayor transparencia del gobierno vasco en aras a que las

no sujetas a órdenes o decretos reguladores también se publiquen en el boletín oficial además de remitirse al parlamento vasco para su conocimiento

y es lo que todo el mundo conoce y sabe qué es en este caso nos congratulamos de que su partido también haya pensado como el señor erkoreka apoye esta reforma

y simplemente agradecer al resto de los grupos la transaccional a la que hemos llegado en aras repito a esa mayor transparencia para los ciudadanos muchas gracias

estamos de acuerdo con los criterios de transparencia que implica

estuvimos de acuerdo en la comisión y trabajamos a favor de que esto se incorporase

eskaintzeko hala nola laug telefonia telefonía de cuarta generación

antena hiru telecinco sogecable veo zazpi net televisión eta

señor aguirre porque efectivamente creemos que se han adoptado las decisiones

consensuadas con el sector se adecuaban a los tiempos como usted sabe y como todos saben el plan técnico nacional de la televisión digital terrestre regula la liberación del dividendo digital

en todo momento minimizar las molestias a los ciudadanos para que sigan viendo todos los canales de televisión pero esto tiene

de facilitar una vía de banda ancha etcétera que va a revolucionar también el uso

va a tratar de minimizar la brecha digital y va a contribuir efectivamente a que se

que están esperando también todos los ciudadanos

ustedes lo saben porque yo creo que de esto se habló ya en las cortes generales y en el congreso de los diputados

un seguimiento al proceso a través de la comisión de coordinación y seguimiento de las actuaciones para la liberación de este dividendo digital

o sea hay que decir y yo creo que es bueno que se sepa aquí que todas las decisiones que se han tomado se han tomado de acuerdo con el sector incluidas las comunidades autónomas

ampliar el plazo aquel plazo que finalizaba a treinta y uno de diciembre se determinó ampliar ese plazo de emisión simultanea de los canales

mediante el real decreto que finaliza el treinta y uno de marzo de dos mil quince esa prórroga

con todos y de acuerdo con el sector se atendió una solicitud del sector que consideraba

era el más adecuado para poder completar el proceso de adaptación de las instalaciones de recepción en todos los edificios afectados la liberación

aquí se está cumpliendo un mandato europeo y en toda europa se fijó fin

como fecha definitiva

aquí efectivamente y por petición del sector y de los agentes implicados efectivamente se decidió ampliar por tres meses ese plazo

y supondrá importantes beneficios estamos convencidos económicos y sociales para la ciudadanía ya que efectivamente esa tecnología implica

con un mejor servicio en todos los edificios y una mayor cobertura geográfica lo que decíamos antes mayor cobertura geográfica que va a reducir

que es beneficioso para el ciudadano y que efectivamente no estamos ante un problema que tenga la importancia que ustedes le dan aquí al traer y pedir una nueva prórroga el ministerio de

ya recordó además a los ciudadanos a través de una campaña específica la necesidad de adaptarse

de cara a esta prórroga del treinta de marzo además primero

cosa que usted sabe que ya no se va a producir pero además

del país vasco usted sabe además que vamos muy por delante del resto de españa estamos por delante en la adaptación con lo cual aquí ya no se genera ningún problema de hecho en el ámbito de las negociaciones usted sabe también que se ha venido manteniendo con francia y portugal ha sido una exigencia por mandato europeo de francia

en las zonas limítrofes en concreto las que nos afectan a nuestra comunidad bizkaia y gipuzkoa se ha tenido que adelantar ese proceso por exigencias

de francia porque efectivamente en europa se determinó

no podían interferir en el avance de esa banda ancha en los países vecinos

se han realizado ese cese de emisiones de las estaciones fronterizas que estaban afectando a la prestación del servicio de esas comunidades móviles en los países vecinos como le digo

ningún tipo de incidencia técnica ni social varios

centros emisores en el país vasco que afectan a setenta y cinco municipios como ustedes decían de bizkaia y de gipuzkoa

no ha ocurrido nada no ha pasado nada estos ya van por adelantado y no ha ocurrido nada en san sebastián

de liberalización en el país vasco como le digo va muy adelantado se está produciendo de una manera controlada se está produciendo de una manera en la que no se han apreciado

de la coordinación internacional con francia se han anticipado en esa liberación ya

para más de seiscientos mil ciudadanos del país vasco por tanto un tercio de la población

además los datos de los que dispone la administración el gobierno si estábamos hablando hace dos meses

por encima del setenta por ciento en el conjunto de españa en el país vasco

hablaban de una adecuación por encima del ochenta por ciento entonces estamos convencidos de que al finalizar este plazo la adecuación en euskadi en relación con el dividendo digital y con la nueva situación alcanzará a cerca

habrá superado el noventa y cinco por ciento de los casos y estaremos ya

en las próximas semanas por eso no entendemos que haya necesidad de ampliar el plazo además tratándose de euskadi ustedes saben no sé si lo saben pero yo creo que lo deberían saber que la propia e i te be

por la nueva situación es la que decidió de motu propio sin llegar a cumplir el plazo del treinta y uno de marzo apagar antes e i te be ya ha decidido se puede ver apagó además oiz que era preciso apagarlo por la coordinación con francia

por esa coordinación con francia ha apagado más centros que podría haberlos mantenido en simulcast hasta el treinta y uno de marzo el propio ente público ha apagado más centros es más en la propia sociedad itelazpi no entienden por qué se esta reclamando una nueva prorroga entienden que se está produciendo todo el proceso sin ningún tipo de incidencia que euskadi además está en condiciones de cumplir los compromisos en relación con esa fecha del treinta y uno de marzo y por eso le digo tanto e i te be e itelazpi trasladaron ya a la este órgano nacional que todo iba bien e incluso

no entienden por qué el pnv está en este momento tratando de buscar esta nueva prorroga cuando aquí todos los organismos afectados

además los edificios las comunidades particulares ya se pusieron las pilas ya hace mucho tiempo y estamos en condiciones de afrontar con éxito esta nueva situación según fenitel

al final de febrero como le decía desde luego los datos del país vasco superaban ya más del ochenta por ciento de adecuación y estaban convencidos de que se aproximarían al cien por ciento

este mes de marzo con lo cual nosotros

primero se dio la información suficiente y la información adecuada con la antelación necesaria y además el gobierno ha puesto un plan de ayudas creo que además se ha tomado

en otros países de nuestro entorno el gobierno ha puesto en marcha ayudas ayudas que han podido beneficiar a todas aquellas comunidades de particulares que han querido efectivamente acogerse a las mismas por eso entendemos que en este

final de este proceso no tiene ningún sentido retrasar más desde luego la llegada de la banda laug de la banda rápida de la alta velocidad

sí efectivamente el veintitrés de febrero la directora de e i te be compareció

y en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de conocer las dificultades que hay que

que se circunscribe sobre todo a una cuestión técnica aprovisionamiento de

de antenas y por lo tanto nosotros atendemos a esa sugerencia creemos que es un problema técnico como digo no es un problema de voluntad ni de si no simplemente de que en poco más tiempo pueda darse

y es que la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas vascas puedan tener la oportunidad de conectar todos los canales incluidos por supuesto

dos semanas después de la comparecencia de la directora general de e i te be

esta proposición estamos discutiéndolo casi en la recta final del asunto pero en cualquier caso vamos a votar a favor esperando que

de salir aprobada como creo que va a ser así esta proposición tenga más suerte con el gobierno de españa

señor oyarzabal usted ha mezclado todo ha mezclado las fechas porque efectivamente yo lo que señalaba aquí es que la unión europea hace ya cinco años dijo qué frecuencias había que utilizar para tdt qué frecuencias para

y también le he señalado aquí que ya en diciembre del año dos mil doce

tenía preparado un borrador de real decreto para la liberación del dividendo digital

septiembre del año dos mil catorce hace seis meses sin hablar con los operadores

no tenían amplificadores suficientes y por lo tanto no es una cuestión que la población no se haya puesto las pilas es que la población que ha pedido el reemplazo

no ha tenido oportunidad porque los antenistas no tenían el material necesario

hace un momento lo que digo es que ha habido falta de planificación por parte del gobierno del partido popular de madrid y yo le voy a leer una parte del decreto que utilizó redactó en último momento el veintiséis de diciembre del año dos mil catorce para aplazar la fecha del apagón dice la ley general de la comunicación audiovisual siete barra dos mil diez consagra el derecho de todas las personas

para la consecución de dichos objetivos y lo configura como servicio esencial de interés general por todo ello se hace necesario adoptar con urgencia la medida de ampliar la fecha límite en la que realizar la completa liberación

de adaptación de los sistemas de recepción de los edificios y garantizar que la población pueda disponer de acceso a la oferta completa de servicios de comunicación audiovisual

que se iba a utilizar para telefonía móvil y el resto

en septiembre del año dos mil catorce previendo el apagón en diciembre de dos mil catorce no tiene mucho sentido yo tengo los números que el ministerio publicó aquí

en bizkaia y en gipuzkoa a fecha de finales de febrero de veintiocho de febrero cuarenta y uno mil instalaciones han sido realizadas faltan sei mila lo que he dicho yo antes un diez doce por ciento de antenas que todavía

apagón de esas frecuencias entonces lo que pedimos aunque sea tarde

que no va a ser posible me imagino que no porque ya el ministro creo que le dio la respuesta a algún parlamentario nuestro

pedimos que se aplique la misma lógica y que se garantice el acceso

a todos los hogares ya que es un servicio público esencial en castellano y en euskera

grupo socialista al señor maneiro y a los ausentes de hoy a euskal herria bildu

y como titulaba un diario el economista en enero

europa planifica su segundo dividendo digital mientras españa aún no ha terminado el primero yo pediría

ha concedido a euskal telebista una frecuencia de emisión que va a desaparecer otra vez

se hagan las cosas un poco mejor tal y como lo están haciendo en francia el consejo superior del audiovisual que ya ha empezado a hablar con todos los actores

podríamos haber hecho las cosas mejor todo es mejorable en esta vida pero efectivamente mientras en otros países hacían los deberes hace cinco años en españa el gobierno socialista no los hizo y llegó el partido popular

con el retraso en españa porque los socialistas no habían hecho los deberes a tiempo pero nosotros los hemos tratado de cumplir y hemos tratado de ponernos en plazo y ustedes ahora lo que quieren es retrasar dicen no oiga es que en europa ya van por delante y van a empezar con la segunda y nosotros no hemos terminado la primera y ustedes lo que están pidiendo aquí es que retrasemos la primera no oiga

este paso a esa nueva banda estamos convencidos de que esto es un paso importante primero hay cinco razones fundamentales se las he explicado

en internet estamos hablando de laug y de otras cosas no solo de

ahora un canal menos de televisión durante semana y media no estamos hablando de eso

que tenemos que cumplir tercero las decisiones que se han tomado ya han sido obligadas porque ese mandato europeo y nuestra comunidad limita con francia pues

fronterizas en europa cuarto porque los beneficios económicos que va a reaportar

además de reducir la brecha digital como hemos dicho y cumplir con

que planteaba alcanzar en dos mil veinte la cobertura de banda ancha de treinta

para todos para el país vasco también para el conjunto de españa

y quinta razón le he dicho que si la propia e i te be ha adelantado el apagado del

qué sentido tiene que ahora planteemos que el gobierno de españa plantee una prórroga para toda españa si la propia e i te be aquí ni siquiera

a trabajar antes y ha cerrado muchos centros con antelación nosotros estamos convencidos de que esa banda

se está utilizando para la cuarta generación de telefonía móvil en españa

va a permitir que el sector económico español siga a la vanguardia en europa y lo está en telecomunicaciones no vengan ustedes aquí a contar que estamos a la cola no

ustedes no cuenten aquí otras historias que no son reales y que no son ciertas las operadoras de telecomunicaciones invierten anualmente en españa unos cinco mil cuatrocientos millónes de euros y generan más

todos los estudios de los expertos dicen que se seguirá creciendo que este sector va a seguir creciendo y va a seguir generando valor añadido a su alrededor como el millón de puestos de trabajo cualificado que se han creado en nuestro país alrededor del diseño de aplicaciones en dispositivos móviles en los últimos años eso va a seguir creciendo

de país también para el país vasco de igual manera

y con la posibilidad como ustedes saben de mejorar el teletrabajo etcétera la reducción

de llegar a todas las zonas geográficas aquellas que en este momento tienen un vacío en relación con ello estamos convencidos que va a facilitar el trabajo también de muchas otras empresas nos aproxima al objetivo de esa agenda digital y termino ya señora presidenta y estamos convencidos además

que esto va a generar esa penetración de banda que supone un incremento en el producto interior bruto

entre el cero coma nueve por ciento y el uno coma cinco por ciento están diciendo los expertos que va a suponer de incremento del

y también en euskadi no podemos parar esto no podemos pararlo ahora simplemente porque estemos además de que estamos por delante del conjunto de españa porque estemos en el noventa y ocho por ciento y porque afecte a determinados edificios

ver la televisión señor aguirre no nos jugamos aquí ver las televisiones nos estamos jugando mucho más y nos estamos jugando seguir a la vanguardia de europa

mire señor oyarzabal cuando no se tiene voluntad política de que

tengan la posibilidad de conectar con todas las televisiones cualquier disculpa es buena

balones fuera y echar la culpa a otros mire usted lo mismo que se hizo una prórroga el treinta y uno de diciembre hasta finales de marzo se puede hacer dos meses todas las razones que ha dado usted ahí abajo no sirven para nada

sino simplemente para justificar una actitud política que ustedes tienen la nula voluntad de que esto la posibilidad de conectar

sea por parte de toda la ciudadanía vasca nada más eskerrik asko

los socialistas tenemos esta mañana otra iniciativa fieles a nuestra tradición prepositiva se plantea que los locales vacíos dependientes del departamento de empleo vivienda políticas sociales que en respuesta planteada a nuestro grupo planteaban una cifra de unos ciento treinta y uno locales nosotros hablábamos en la iniciativa de destinar a aquellos que lleven más de doce meses vacíos a

todo aquel que haya tenido ocasión en algún momento de plantearse una iniciativa de emprendimiento y que carezca de recursos sabe que una de las necesidades más críticas es la de tener un espacio donde desarrollar

y entendemos que un parque importante de locales vacíos puede destinarse perfectamente

una utilidad de esta naturaleza entendemos que es una buena idea porque entre otras cosas las enmiendas recogidas por parte de los grupos no discuten para nada la idea central de la proposición y por lo tanto no habiendo discrepancias de fondo pensamos que efectivamente esto corrobora

que mejora la iniciativa original porque ya no se dedicarían solo los locales que lleven más de doce meses vacíos sino todos aquellos y además se introduce una cautela que nos parece importante y es la de sujetarlo a un programa que tome en consideración cada proyecto y en atención al mismo se pueda llevar a cabo

desde luego un buen acuerdo que en realidad en fin toma como base la enmienda de totalidad del partido nacionalista y en ese sentido

constituye casi casi un allanamiento al planteamiento del partido nacionalista vasco

que no está escrita que es la que nos parece más importante para suscribir en los términos en los que plantea el partido nacionalista su enmienda de totalidad trasladarla prácticamente

casi con total fidelidad a la enmienda de transacción y es la necesidad de que este acuerdo se cumpla

este parlamentario que habla ha intervenido en unos cuantos debates y en propuestas tanto de su grupo como de otros grupos

que a la vista de la relación que nos remite el gobierno sobre cumplimiento o más bien diría yo incumplimiento de los acuerdos

con decepción que la mayor parte de los acuerdos que este

o no aparecen en la relación o hay alguna razón en fin deletérea por la cual no se cumplen por lo tanto hemos abrazado hemos abrazado

que este acuerdo y los términos del mismo se lleven a cabo que el hecho en fin de buscar una discusión semántica sobre los términos de una redacción para ver

en estos debates previos a la votación nos parece más importante que se destinen esos ciento treinta y uno locales que aparecen en la respuesta del gobierno

que el hecho de en fin discutir cuestiones conceptuales o cuestiones semánticas por eso hemos abrazado sin ningún tipo de discusión

de contrariedad los términos que plantea por otra parte es una redacción que tampoco nos ofrece dificultad es una buena redacción

que las tesis del adversario pueden estar bien formuladas por esa razón es por lo que planteamos esta

vacios puedan destinarse a proyectos empresariales pedimos la adhesión a aquellos que no la suscriban

desde el escaño para explicar que nuestro grupo ha firmado la transacción que acabamos de presentar a la mesa entre el grupo socialista

y el grupo popular nosotros desde luego creemos que

para dar salida a muchos de esos locales situados en promociones públicas y a través de la fórmula que se considera en este momento más apropiada

creemos que es importante que desde el gobierno vasco y de acuerdo también con los ayuntamientos se impulse ese trabajo para facilitar

de microempresas y de nuevas empresas esos locales esas nuevas posibilidades

gracias presidenta yo también abrazo la transaccional que finalmente hemos firmado creo que es un buen acuerdo y por lo tanto además de firmarla y abrazarla la votaré gracias

egun on guztioi la percepción que tenemos nosotros de nuestro grupo con el planteamiento que nos ha hecho el partido socialista es que es un tanto una postura si me permite la expresión señor itxaso en tono cariñoso un poco quevedesca

con esta iniciativa el partido socialista está haciendo lo que aconsejaba quevedo

de mujeres que para que parecía que las mujeres les seguían les aconsejaban situarse delante de ellas

y ustedes para poder decir que el gobierno actúa a impulso suyo presentan iniciativas sobre aquellas cuestiones en las que ya está trabajando el gobierno todas las posibilidades que

como digo desde hace varios meses atrás

solairuetan daude estos locales se hallan repartidos por toda la geografía de la comunidad autónoma del país vasco en los tres territorios y se ubican también en los principales municipios

para orientarlo a la consecución de los intereses públicos generales el actual gobierno tiene entre sus objetivos centrales la actividad de fomento dirigida

por su parte alineado en la consecución de este objetivo el departamento de empleo desde el área de vivienda viene trabajando en la dinamización del stock de locales comerciales en su poder resultantes

lo que ocurre es que se trata de inmuebles que desde un punto de vista comercial en muchos casos son poco atractivos por su ubicación geográfica respecto de las zonas más dinámicas

del punto de vista económico a los que hay que añadir esta dificultad

hay que hacerlo a nuestro juicio desde una triple finalidad en primer lugar

para reforzar las políticas públicas de vivienda en segundo lugar con el objetivo de disminuir los gastos que generan el mantenimiento de ese parque público sin ocupar y finalmente la de obtener una rentabilidad social dirigida

las fórmulas de dinamización pueden ser varias el alquiler con alternativa de apoyo

la transformación de locales en viviendas reservar los locales para entidades con fines de inserción local y existiría una cuarta posición que consistiría en realizar

para la comunidad en un periodo de diez años por ejemplo y en función del mismo establecer unos precios de venta

puramente económica pero en principio no es ese el objetivo sino el de orientarlos como decíamos para la consecución de ese objetivo de facilitar la creación

de puestos de trabajo hemos alcanzado

porque creo que coincidimos en esencia más que en algunas cuestiones de matiz agradecer a todos ellos que presten

para apoyar la superación de esta etapa de riesgo inicial que plantean los emprendedores los que quieran crean una empresa en el momento inicial como digo facilitándoles

en forma de soporte físico y en la medida de lo posible teniendo en cuenta como decía las circunstancias socioeconómicos actuales

un producto con unas características y unas condiciones que servirán para reforzar aquellas otras

destinadas en modo específico a la creación de empresas desde otras áreas del gobierno

gracias a los grupos que participan en la transacción

delante en todo caso detrás buscando el cumplimiento de los acuerdos que emanan de las mayorías de este parlamento solo que en esta ocasión hemos decidido que la mayoría la conforme también con ustedes para verificar que

comenzaré diciendo que hoy es un día importante aunque este pleno vaya así de rápido y diferente a otros

en su día en el debate presupuestario la pobreza energética acaba siendo reconocida como una realidad más dentro de la pobreza de la sociedad vasca

podrá hacerse efectiva y empezar a ayudar a las familias sumidas en esta situación por tanto

y agradecer de antemano al señor maneiro las facilidades puestas por su parte para poder llegar a la enmienda transaccional que los dos grupos hemos firmado pero estando de acuerdo y de forma positiva con lo que aquí hemos firmado creo que el gobierno vasco

por un lado más de un año de incumplimientos porque el veintisiete de febrero se aprueba en este pleno una proposición no de ley en la que se le instaba al gobierno vasco a cumplir con su trabajo en lo que tenía que ver con la pobreza energética

nada por otra parte negación por parte del gobierno vasco y del partido que le apoya de esta nueva cara de la pobreza en diferentes ocasiones creo que en nueve

como una nueva realidad en la sociedad a la que había que poner soluciones y por parte del gobierno vasco y del partido nacionalista vasco siempre un no y por otro la crítica al voto contrario por parte del partido nacionalista vasco en la mesa a la tramitación con carácter de urgencia de esta proposición no de ley lo que nos lleva a debatir esto un veintiséis de marzo con la primavera ya comenzada cuando realmente la pobreza energética

que las familias en este caso vascas no pueden hacer frente pero bueno

reconociendo este acuerdo alcanzado sabiendo de antemano que no va a salir por la posición del partido nacionalista vasco

parece que sí que va a salir un cambio de última hora estas son cosas del directo

pues sigo porque me vale igual la intervención pero vamos le agradezco al señor carro que haya firmado ahora la

incluidos por el partido socialista de euskadi en el presupuesto reconocemos de inicio que puede que no sean suficientes pero sí son el primer paso para que la administración pública vasca sea capaz de dar soluciones a estas familias el grupo parlamentario socialista incluyó este tema en la agenda parlamentaria de diferentes formas

a través de proposiciones no de ley en plenos ordinarios y mediante

y la respuesta es verdad que no era la que los socialistas pretendíamos pero lo importante es que hoy el escenario es otro

que las informaciones recibidas los informes y las demandas del tercer sector nos dibujan una realidad clara y evidente como todos sabemos hablamos de pobreza energética cuando un consumidor vulnerable dedica más de un diez por ciento de sus ingresos al pago de consumo de energía con los últimos datos sabemos que en españa hay más de siete millónes de familias

y en euskadi aunque reconocemos que el porcentaje de familias que sufren esta situación es menor es cierto que en este último invierno no ha dejado de crecer pero hay más

creemos que en este tema como en otros hemos llegado tarde pero lo importante es quehoy se pone el primer punto para dar solución al problema

seguramente contamos con el mejor modelo de protección social de toda españa un modelo que se sustenta en nuestra capacidad de autogobierno hasta convertir en derecho subjetivo el acceso a una renta mínima pero lo cierto es que aunque nuestro sistema pueda ser el mejor

cerca del cuatro por ciento de la población vasca está en situación de pobreza energética la crisis económica no termina con las consecuencias en las familias en este caso las vascas los salarios continúan bajando mientras la energía no para de subir las circunstancias laborales de las familias están muy lejos de las deseables

debemos dar solución a quienes no pueden pagar las facturas y se ven obligados entre comer pagar facturas o pagar otros gastos en una pregunta oral al lehendakari sobre este tema

para que nadie se quede sin poder calentar su casa o su comida por no poder pagarlo y es aquí donde se encuentra esta proposición no de ley desde el primer debate sobre este tema hace más de un año el escenario ha cambiado sustancialmente y el trabajo del tercer sector en este campo ha sido fundamental

por eso pedimos al gobierno que desarrolle un convenio con quienes conocen la realidad de esta situación con quienes saben quiénes son los demandantes de pobreza energética y quienes llevan mucho tiempo haciendo frente a esas facturas el segundo punto de la iniciativa

ejerza ejercicios de mediación con las empresas implicadas en el tema y no permitan que ninguna familia se le corte la luz o el gas y el tercer punto de la enmienda transaccional

que se sabe que sufren pobreza energética no me voy a extender en la explicación del tema porque

creo que se ha desarrollado ampliamente qué es y quiénes son los afectados por pobreza energética

incorporación a la enmienda transaccional parece que este convenio con el gobierno va a ser una realidad

y confiar en que a partir de ahora nunca más haga falta

una partida nominativa a la pobreza energética pero que si hay que volver a hacerlo quizás debiera ser más amplia para poder dar solución a todas las familias nada más muchas gracias eskerrik asko

ciudadana que desde el partido popular tal y como hemos puesto de manifiesto en esta tribuna en reiteradas ocasiones

ámbitos institucionales y cada uno obviamente desde sus competencias creemos que aquí hay margen para poner en marcha

que se derivan de la pobreza energética porque estábamos firmemente convencidos de que el gobierno vasco tiene competencias y que en esta materia no puede echar balones fuera porque tiene competencias que debería

para abordar el problema de la pobreza energética se puede incidir en dos ámbitos de actuación uno de ellos es la reducción del coste de las facturas energéticas

o incidir también en la renta disponible en los ingresos

a las familias que están en una mayor situación de vulnerabilidad y que lo están pasando peor en el escenario de crisis económica

actuar en este doble ámbito y en ese sentido hemos planteado nuestra enmienda ya hace poco también tuvimos ocasión de debatir una iniciativa en relación a la posible modificación de la rgi

el gobierno vasco debe de considerar muy sinceramente y muy firmemente la posibilidad de modificar la rgi para contemplar precisamente las situaciones de las personas que se ven afectadas con la pobreza

de manera que para nosotros y es nuestro punto de vista no se aborde y no se combata tanto como una emergencia social sino como una necesidad básica que es necesario garantizar por eso hablamos de modificar la rgi

se ha centrado el tema en las ayudas de emergencia social pero cuando estamos hablando de las ayudas de emergencia social estamos hablando ayudas

para paliar situaciones excepcionales

hablando de ayudas muy concretas ayudas que sufraga el gobierno vasco pero que gestionan los ayuntamientos estamos viendo como esas ayudas

los ayuntamientos por eso consideramos que no es la solución adecuada y viendo que estamos

ante uno de los prosistemas de protección más avanzados no solo del resto de españa sino de toda europa

cuanto a aumentar la renta disponible de estas personas habría que encuadrarlo claramente

es un derecho subjetivo y por lo tanto se puede exigir en la medida en que se cumplan los requisitos exigidos

estamos absolutamente convencidos de que las ayudas las prestaciones económicas previstas en la ley

deben obviamente destinarse aquellas personas que realmente lo necesitan y aquí estamos hablando de colectivos

aspectos en los que consideramos que se puede incidir como señalaba

energéticas en ese sentido hemos planteado nuestro segundo punto

en los hogares que sufren pobreza energética de manera que se garanticen las necesidades básicas estamos hablando de medidas que puedan implantarse y que vayan encaminadas

la factura energética que los edificios consuman menos y que se haga un consumo más eficiente estamos hablando de medidas que se pueden arbitrar en relación a las cubiertas a las ventanas al uso de electrodomésticos por lo tanto esos son

puntos en los que consideramos que hay que hacer hincapié y son los puntos que quedan plasmados

en una enmienda de totalidad no conozco la enmienda de transacción sé que ha hecho la señora rojo referencia a ella me imagino que al final se habrá firmado o no sé pero

de verla en cualquier caso planteamos una enmienda a la totalidad por no estar de acuerdo con los planteamientos que se hacía por parte del partido socialista proponente de la iniciativa

no me voy a centrar en el grupo eh bildu porque obviamente no forma parte hoy de ningún debate tras la decisión

en la enmienda planteada por el partido socialista que una vez más es repetición

en uno de los anteriores debates que tuvimos en relación a esta cuestión y nuevamente el partido nacionalista vasco siempre haciendo victimismo siempre buscando el enfrentamiento y siempre intentando salvaguardar su ámbito competencial pero luego cuando tiene realmente competencia en una cuestión como es esta pues no quiere afrontar los problemas

y vuelve a apelar a cuestiones al ejecutivo central quiero decir que

medidas por parte del gobierno central en el ámbito energético y medidas muy importantes que desde luego están permitiendo dar

a una situación en estos tres años en este ámbito y sobre todo medidas que había que haber tomado ya hace tiempo que son medidas de carácter

cuestiones concretas del decreto ya en marcha del bono social de la electricidad

del bono social de gas pero esta cuestión está dentro de la tramitación de la ley general de hidrocarburos y por lo tanto es una cuestión que también quedará regulada esperamos que el partido nacionalista vasco que trae ese tema aquí y que tanto le insta al gobierno de españa

a esta cuestión y también todos ustedes saben que se está regulando y se aprobara en breve la regulación del autoconsumo por lo tanto los avances en el ámbito de la legislación estatal están ahí lo que yo lamento es que una vez más

mire a los demás y trate de trasladar las responsabilidades que ellos no ejercen a los demás y por lo tanto no cumplir con sus obligaciones y con sus compromisos de cara a la sociedad vasca en principio mantendremos nuestra enmienda que creo que recoge los dos ámbitos de actuación en los que creemos que se puede incidir y veremos también la posición del resto

sí muchas gracias presidenta buenos días a todas y todos señores

el veintisiete de febrero de dos mil catorce hace más de un año ya se aprobó una iniciativa en relación a esta cuestión en esta misma cámara que fue incumplida por parte de este gobierno aquella iniciativa decía que este parlamento insta al gobierno vasco a que en el ejercicio de la capacidad de autogobierno establezca las medidas que sean necesarias para impedir que ningún ciudadano se le pueda cortar la luz

si se encuentra en situación demostrable de no poder atender sus facturas en especial en las épocas de mayor demanda un texto

a aprobar a finales de dos mil catorce ese mandato parlamentario

por parte de este gobierno demostrando de ese modo su absoluta falta de sensibilidad con miles de ciudadanos que están sufriendo la llamada pobreza energética a día de hoy ciento cincuenta mil familias vascas dedican un gasto desproporcionado doméstica la pobreza energética aquella que padecen aquellas familias incapaces de mantener una temperatura adecuada en sus viviendas afectaba en euskadi en dos mil doce al cuatro por ciento de los hogares lo que se traducía

ya en dos mil trece esta cifra aumentó hasta alcanzar

afectados hoy día son miles de ciudadanos

pobreza energética los que siguen pasando frio especialmente en invierno tal como el actual consejero de políticas sociales reconoció en esta misma cámara hace unas semanas a preguntas de este grupo esto nos parece absolutamente inaceptable

reconozca que hay miles de ciudadanos vascos que han pasado frio este invierno y a continuación diga que sí que efectivamente están actuando tarde y mal

presupuestaria que ustedes firmaron voluntariamente con el grupo socialista y que upyd por cierto también apoyó a pesar de que era

por lo tanto el gobierno ha hecho oídos sordos a la petición de este parlamento de presentar medidas concretas contra la pobreza energética en este caso concreto no podrá acusar a otros gobiernos no podrá acusar al gobierno de españa porque tendrá que mirarse a lo que realmente este gobierno en virtud de las competencias de las que dispone y lo cierto es que ha hecho muy poca cosa o prácticamente nada en relación a esta cuestión ha mostrado por lo tanto insensibilidad en relación a esta cuestión a pesar de los repetidos intentos de varios grupos parlamentarios en hacerle ver la importancia del tema en el presupuesto en vigor se introdujo una partida de doscientos mil euros a paliar las necesidades de las familias vascas que no podían hacer frente

y paliar por tanto la denominada pobreza energética esa partida se introdujo en los presupuestos a finales del mes de enero upyd

al consejero toña sobre el destino exacto que se iba a dar a esa partida económica qué gasto se iban a sufragar

que se verían beneficiados con los recursos disponibles durante el debate presupuestario se argumentó que incluir

y de urgencia lo que justificaba la pregunta de este grupo en el primer mes de vigencia del presupuesto hicimos aquella pregunta por escrito y

nos respondió en ese momento lo siguiente la dirección de servicios sociales del departamento de empleo y políticas sociales

está trabajando en definir y determinar el mecanismo más eficaz de reparto de esta partida

pero a día de hoy no lo tenemos decidido esto fue lo que dijo el día dieciocho de febrero a pesar de que había firmado una transaccional con el grupo socialista para que esa partida pudiera estar

y dos meses después dice que no sabe cómo articular

y decía que estimamos que en un plazo breve de tiempo tendremos las respuestas a las preguntas que nos realiza

nosotros hicimos una pregunta oral al consejero aquí presente

fue muy sincero dijo que estamos trabajando para identificar y determinar un mecanismo más eficaz que el que hemos tenido hasta ahora

que está integrada en el presupuesto llegue a las personas destinatarias lo estaban estudiando el objetivo decía que además compartimos es el de dirigir estas ayudas a otros colectivos que puedan quedar fuera de las ayudas de emergencia social y decía que no es tan sencillo como pueda pensar identificar esos colectivos no es tan sencillo articular los procedimientos para prestar esas ayudas por eso le reitero que estamos trabajando para dar una respuesta lo más adecuada y rápida posible dos meses después el gobierno todavía no sabía cómo articular

afectar y esto yo creo que evidencia la incapacidad de este gobierno para solucionar uno de los problemas esenciales de la sociedad o al menos de miles de ciudadanos vascos energética qué cosas más dijo el consejero el propio consejero dijo que hay ciudadanos que están pasando frío

nos dice que hay miles de ciudadanos que están pasando frío tenemos encima de la mesa

instándonos a que articulemos las ayudas a través de entidades

la tenemos es decir el consejero el gobierno recuerda a una grupo de la oposición que sí que efectivamente tienen una proposición no de ley encima de la mesa esta

es decir da la sensación que este gobierno si no tiene una proposición no de ley planteada por un grupo de la oposición no se mueve y no hace nada en lugar de observar cuáles son

de la sociedad y ciertamente aunque agradecemos la sinceridad de este nuevo consejero nos da la sensación que este gobierno sigue demostrando una inmensa incapacidad para resolver

tal como merece y el consejero realizaba también él preguntas en relación a la cuestión cómo comprobamos que no tienen derecho a percibir ayudas a quién se dirige la ayuda a las personas o a las unidades de convivencia

cómo controlamos la situación económica global de la vivienda qué hacemos con las personas con derecho a ser perceptoras que se han quedado sin ayudas de emergencia por haberse agotado el presupuesto ustedes sabrán qué es lo que tienen que hacer

tendrían que saber exactamente qué hacer con ella y desde luego era una partida presupuestaria urgente que tenía que ser aplicada

no ya el invierno siguiente y decía el consejero como ve

con rigor que llegue realmente a quien esté destinada y en igualdad de condiciones hay que tomar decisiones previas que requieren su tiempo el consejero todavía pedía tiempo el día veintiocho de febrero después de firmar aquella

nos dijo y estoy de acuerdo con usted señor maneiro andamos tarde nosotros nos hacemos responsables de la tardanza yo me hago responsable de la tardanza lo cual ya digo que le honra

aquellas personas que se dirijan a este gobierno atendiendo a esta partida que también esto se ha aprobado no pasarán tanto frio como este año es decir

miles de ciudadanos han pasado frio en euskadi durante este invierno

nos parece inaceptable bien a partir de todo esto el grupo socialista presenta su iniciativa nosotros presentamos una

décimos expresamente cómo tiene que articularse esta partida lo que sí décimos es que este gobierno tiene que ser sensible y tiene que resolver este problema es lo que básicamente decíamos

la censura de este gobierno por no haber actuado de manera más diligente y por haber incumplido multitud de acuerdos parlamentarios en relación a esta cuestión finalmente ciertamente hemos

con el grupo socialista también la ha firmado el partido nacionalista vasco nos alegra pero nosotros queremos que se cumpla y que se resuelva este problema y que se atienda la situación en la que se encuentran miles de ciudadanos vascos no podemos permitir que en el año dos mil dieciséis

vuelva a ocurrir lo que ya ha ocurrido en el invierno de dos mil quince que miles de ciudadanos vuelvan a pasar frio en sus casas como consecuencia de la inacción
de este gobierno gracias eskerrik asko maneiro jauna

luchando contra la pobreza y contra la pobreza energética también

últimamente a lo que es la pobreza energética pero las ayudas para los gastos de agua de consumo de electricidad de gas ya están recogidas en las ayudas de emergencia social qué es lo que hemos añadido este año

entren dentro de las ayudas de emergencia social se habilita esa partida específica

para aquellas familias que tienen pobreza energética pero que no están dentro de las ayudas de emergencia social es decir que no cobran renta garantía de ingresos ni ayudas de emergencia social

y en eso es nuevo y agradezco al partido socialista por esa iniciativa pero llevamos ya diecisiete años luchando contra la pobreza energética

luego eso es una realidad qué ocurre pues que también la propia definición de pobreza energética

así como hay un consenso amplio en identificar a los tres factores

unos ingresos económicos escasos una baja eficiencia energética de las viviendas o unos elevados precios de la energía

a dificultades importantes a la hora de hacer una definición común y de un sistema de medición consensuado teníamos la organización mundial de la salud la definía como la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas

lógicamente esto hace difícil para la administración cuando

que salen fuera a parte lógicamente como bien explicó el consejero y también porque el partido nacionalista vasco es un partido responsable y este gobierno también

y los trabajos que el propio departamento ha hecho

hasta las empresas del tercer sector se encuentran con que es difícil de establecer unos criterios y por eso la enmienda de transacción que no estaba en la enmienda inicial del partido socialista

se ha recogido lo cual agradezco en la nuestra sí que estaba recogida es que había que establecer estos criterios por qué porque cuando se enfrentan a la hora de cómo reparten esos doscientos mil euros

estos grupos del tercer sector

de cómo poder repartir esas ayudas entonces hay que establecer esos criterios eso es difícil y debido a esa dificultad

no voy a analizar por qué el partido socialista la pueda traer aquí o no pero es cierto que eso es una dificultad que creo que

a la hora de establecer esos criterios y para poder dar esa línea de ayudas bien respecto a cómo estamos

ya no es cuestión de ver lo que pueda decir el propio gobierno sino lo que puedan decir los informes ya sea el de cáritas el séptimo programa marco

cuando establecen esas comparativas a nivel del estado español la renta de garantía de ingresos del país vasco da lugar a un programa diferente

de la renta mínima de inserción de autonomías es decir tenemos un sistema bueno que podemos mejorarlo y eso agradezco al partido socialista con lo cual en esa línea es en la que debemos de trabajar

y un poco contestando a la portavoz del partido popular que critica que no atendemos a nuestras competencias es que no hay que olvidar

en sus directivas del dos mil nueve sobre lo que es la regulación eléctrica y el gas y explican claramente que hay que hacer el bono social

aunque la señora portavoz del partido popular nos diga que está por hacer en el sistema eléctrico ya está hecho desde el dos mil trece

y podríamos sacar pero yo creo que no viene al caso de cuántas veces han dicho que van a poner el bono social del gas y espero que efectivamente pues bueno

posible que se pueda regular a nivel del estado español el bono social del gas eso es importante porque eso sí que también es una medida muy importante para que haya muchas familias del país vasco

que en nuestras tres capitales la mayor parte más del sesenta por ciento de todas nuestras familias

y también el que no se les pueda cortar esa línea de gas o de electricidad en circunstancias que les aparezcan

y eso sí que había que trasladarlo aquí pero eso no se ha hecho luego

a la totalidad aparezcan toda esa serie de requerimientos al gobierno de españa del bono social de un derecho básico

y luego no hacemos omisión a nuestras responsabilidades claro que están ahí y lo tienen en los puntos últimos

nosotros ya lo tenemos recogido y sigamos trabajando y luego ya en nuestro último punto es lo que comentamos cómo mejorar lo que es la enmienda

y hemos llegado a un acuerdo de transacción con lo cual estamos contentos por seguir dando un paso más

presidenta muy brevemente para decir que señor carro no llevamos diecisiete años trabajando para erradicar la pobreza energética es justo ser capaces de decir que es lo que hemos hecho bien que se han hecho muchas cosas bien por parte de quienes han tenido el privilegio de poder gobernar el país vasco pero hay muchas cosas que no se han hecho unas porque no han querido hacerse

y otras porque efectivamente no formaban parte de la agenda social política de ese momento

porque si hubiéramos estado trabajando durante diecisiete años para erradicar la pobreza energética euskadi

que hubiera sido capaz de dar respuesta a este problema y no lo tenemos y hubiéramos sido capaces de trabajar por otro tipo de energías energías más baratas energías más accesibles hubiéramos trabajado por el autoconsumo y estaríamos en un sistema energético y como todos hemos reconocido aquí un millón de veces el debate energético es un tema que es una asignatura pendiente para todos y de todos por lo tanto se habrán hecho muchas cosas pero desde luego trabajar para poner medidas para erradicar la pobreza energética no otra cosa es lo que

que eso es otra cosa y que yo he dicho en mi primera intervención que yo que el sistema de protección vasco es privilegiado si lo comparamos con el resto de españa sí eso es verdad pero es verdad que la pobreza energética

como usted bien ha dicho para esas personas que ustedes han negado durante nueve iniciativas socialistas

cubría aquellas familias y por eso el partido socialista y otra vez hasta nueve veces trajo a esta cámara la pobreza energética para que pudiéramos ser capaces de reconocer que había un colectivo de la sociedad que quedaba al margen de ese maravilloso sistema de protección social vasco por lo tanto llamemos a las cosas por su nombre euskadi va por delante de muchas cosas si la comparamos con otras comunidades autónomas es verdad

no y cada uno asumimos nuestra responsabilidades cada uno lo que le toca el partido socialista también ha gobernado euskadi y tampoco voy a decir

en el primer punto del programa de gobierno esto porque no es verdad pero tampoco es verdad porque la crisis económica no era la que es hoy

porque ni los sueldos estaban hace cinco años igual que hace quince ni que el año pasado ni que espero que mejoren de cara a partir de ahora

pretender ser lo que solucionamos todo cuando verdaderamente no lo es por otra parte decir

que esta iniciativa está en marcha yo sé que el gobierno vasco está trabajando en ello sé que se ha puesto en contacto con el tercer sector me parece bien me parece responsable además porque creo que es lo que debe hacer para ser capaz

y por lo tanto lo único que les puedo decir es que agradezco a quienes han firmado el acuerdo creo que a partir de hoy

es verdad que al tercer sector llega a un colectivo de personas que no llegan a la administración y son ellos los que son capaces de reconocer qué familias son las que necesitan porque ya están

y eso lo sabemos todos y los que mejor conocen a ese colectivo son ellos y por lo tanto es poner en manos del tercer sector aquello que ya están haciendo pero con un apoyo de la administración

únicamente esperar que el gobierno sea capaz de concluir pronto este convenio con el tercer sector como digo y que sea una realidad la puesta en marcha de esa

siempre reclamando competencias confrontando por

competenciales viendo continuamente fantasmas donde no los hay y cuando tiene competencias en una materia claras en las que adoptando medidas se puede mejorar claramente la calidad de vida de los ciudadanos vascos

nuevamente el gobierno de españa porque parece ser que este gobierno nuevamente en determinadas cuestiones estratégicas está absolutamente

parece mentira que el partido nacionalista vasco que se erige tan defensor de nuestro autogobierno y de nuestras competencias luego cuando tiene competencias no se digna

en marcha medidas de acuerdo al ámbito competencial que le corresponde mire señor carro se lo he dicho muy claro decreto del bono social de la electricidad decreto del bono social de gas en tramitación y esperemos que la ley ustedes no

del autoconsumo españa saca adelante el mercado común energético

eso es una noticia reciente una firma conjunta con francia portugal y la comisión europea

pasa de las declaraciones a los hechos cosa que no hace el gobierno vasco teniendo competencias se le llena la boca de que tenemos uno de los mejores sistemas de protección social

tirados porque no cubre todas las solicitudes y luego es incapaz de hacer las modificaciones pertinentes en la renta de garantía de ingresos hay que hacerlas porque son un derecho subjetivo para atender estas situaciones de las personas que lo están pasando peor o por no hablar de los recortes sucesivos

y a las ayudas a la conciliación que vemos que nuevamente las ayudas de este año no van a sufragar las solicitudes que se van a pedir este año sí lo digo señora arregi para contextualizar y para ver que este gobierno que tiene competencias

luego cuando puede hacer cosas no las hace y le entra la parálisis

nuevamente se vuelve a olvidar de las familias vascas y de las familias vascas que lo están pasando peor y mire señor carro es que el sistema eléctrico viene de grandes desequilibrios como usted sabe

señores del partido nacionalista vasco apoyaron porque entonces apoyaban todas las decisiones del señor zapatero en madrid por lo tanto algo de corresponsabilidad ya tienen

que se tomaron también en este ámbito y por recordar cómo se incrementaban las tarifas eléctricas

cómo subía el precio para las familias medias un sesenta y seis coma veintiséis por ciento cómo se acumuló una deuda de veintisiete mil quinientos treinta millónes que se trata de paliar

y que si no se hubieran puesto medidas como ha puesto medidas este gobierno hasta ahora para proteger al consumidor

cuarenta y dos por ciento por lo tanto se puede decir claramente que se ha frenado el tarifazo eléctrico

y reducir el déficit más del cuarenta por ciento entre dos mil ocho y dos mil catorce ese déficit que teníamos de esos

que es de lo que se trata el precio sea más competitivo porque es algo esencial para el sector eléctrico y para que se siga generando empleo es decir el partido popular

ha hecho reformas estructurales varias de ellas en el sector energético

no hace nada está paralizado y encima trata de que otros gobiernos hagan para

tienen mucho que hacer por las familias vascas y está claro que no es una de sus preocupaciones prioritarias a tenor cuestiones que estamos viendo recientemente con las decisiones que están adoptando finalmente decir que la enmienda de transacción en el primer punto nos vamos a abstener

que hay que ejecutar pero creemos que el debate hay que encuadrarlo dentro de la renta de garantía de ingresos que es un ámbito competencial propio y donde hay margen y en los

ponía el partido popular en su enmienda los vamos a suscribir eskerrik asko garrido andrea

sí gracias decía el señor carro que llevamos diecisiete años luchando contra la pobreza nosotros reconocemos ya bastantes años en una situación

no hay ningún tipo de duda disfrutamos de un buen sistema de protección social la renta de garantía de ingresos

en fin infinidad de datos que nos dicen esto que efectivamente estamos mejor que en el resto de españa hay que reconocerlo hay que decirlo es exactamente pero aún teniendo un buen sistema vasco de protección social lo que se plantea es que hay que atender también a aquellas personas que quedan fuera de este sistema

consecuencia de la crisis económica consecuencia de los recortes sociales que se han impulsado por el gobierno de españa y por este gobierno consecuencia de una política energética que no ha sido en absoluto razonable por culpa por cierto del partido popular y del partido socialista y consecuencia de multitud de decisiones políticas o consecuencia de la falta

lo cierto es que en los últimos años la pobreza ha crecido en euskadi ya al margen de lo que haya ocurrido en el resto de españa la pobreza ha crecido en euskadi en los últimos años la pobreza en general la pobreza infantil y la pobreza energética y que andamos tarde también es un hecho evidente porque resulta que estamos dejando atrás al parecer nada mas y nada menos que siete años de crisis y después de estos siete años todavía estamos debatiendo

por eso yo estoy de acuerdo con lo que decía el consejero andamos tarde efectivamente andamos tarde porque hay miles de ciudadanos que a pesar de que tenemos un buen sistema de protección social han padecido frío en sus casas durante el último invierno y yo creo que

se podrían haber hecho hace ya algunos años y desde luego durante los últimos meses ha habido iniciativas parlamentarias de varios grupos incidiendo en esta cuestión

ni criticar al gobierno porque sí nosotros queremos que este problema se resuelva que se resuelva cuanto antes y que se resuelva de manera razonable es de hecho lo último que nos preocupa y se firmó una partida presupuestaria

euros y yo no dudo que puedan existir efectivamente dificultades

y para el establecimiento de criterios correcto hay dificultades bien pero los grupos de la oposición lo que tenemos que hacer es intentar instar al gobierno a que supere todas esas dificultades y cuanto antes se articule esa partida y se pueda atender a tantos miles de ciudadanos que están sufriendo tanto y ya

no tanto a cuáles son las iniciativas que se aprueban o las transaccionales que se firman si no a lo que efectivamente se termina haciendo porque el señor carro ha dicho este

es un punto de inflexión bueno no sé si la firma y la aprobación de una enmienda de transacción de estas características es un punto de inflexión lo veremos si efectivamente se aplica y se aprueba cuanto antes por favor que sea cuanto antes que sea cuanto antes yo creo que euskadi tiene recursos financieros suficientes a este problema creo que sí creo que se puede hacer y es lo único que nos mueve que cuanto antes

y llegue a los ciudadanos que están padeciendo frío y pobreza energética

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora rojo entiendo su discurso

si usted hubiera nacido ayer o a partir del dos mil doce

han tenido su responsabilidad en los gobiernos de españa no han nacido ayer y lógicamente este es un tema que ni en autoconsumo ni en lo bonos del gas

y sus gobiernos cuando ustedes gobernaban no lo han hecho señora del partido popular vamos a hablar de hechos

la directiva europea dos mil nueve estamos marzo dos mil quince son seis años y todavía no está

que ya lo han metido en la enmienda vale perfecto en esta nueva ley

me imaginó yo que dado que noviembre son elecciones generales por fin las familias

y eso aquí lo notaremos y mucho si quería también

en cuanto a familias vascas le voy a seguir hablando de hechos desde el veinticinco de febrero el departamento de empleo

y a través del de hacienda ya ha entregado al ayuntamiento de vitoria gasteiz el dinero para las ayudas de emergencia social veintiseis de febrero ha pasado un mes

vitorianas que todavía están esperando a cobrar ese dinero cualquier gestor de un ayuntamiento sabe

qué es lo que puede y no puede abonar y esas ayudas las podía incluso haber adelantado porque sabe

luego eso es gestión eso es una mala gestión de su partido en el ayuntamiento de vitoria

ayudas de emergencia social donde está también el agua la electricidad la comunidad

que estamos viviendo en vitoria con ustedes señor maneiro

como siempre que se desagrega algo es complicado realizarlo

con esta nueva iniciativa los organismos del tercer sector si tienen que dar unas ayudas que es para gente que no está

y lo que se le exige desde el poder público es que haya un chequeo para ver si reciben esas ayudas

porque como usted bien ha dicho y le agradezco tenemos un buen sistema de protección social y como queremos seguir teniéndolo lo que necesitamos

y eso es algo que toda esa desagregación cuesta y de ahí que hayamos establecido que hay que generar